subrayar que cada una de las organizaciones de osakidetza ha realizado un informe propio de su evaluación

salud mental y emergencias y ochenta y seis unidades hospitalarias se han realizado cuatrocientos sesenta y cinco entrevistas a pacientes cuya lengua de preferencia era el euskera se han realizado cuatrocientos sesenta y cinco llamadas telefónicas a otras tantas unidades asistenciales prioritarias de acuerdo al plan

más de cien jefaturas de servicio y más de doscientos profesionales

con participación de trescientos veintidós profesionales y cincuenta y seis representantes sindicales del trabajo de análisis se puede resumir como principal conclusión

de los derechos lingüísticos sin duda hay margen de mejora y camino por recorrer

y los logros alcanzados importantes el incremento de pacientes que han elegido el euskera como lengua de preferencia ha alcanzado ya

y el incremento de profesionales bilingües es uno coma dos por ciento

de cantidad de mujeres víctimas de violencia machista pero esta pregunta tiene un nombre propio

vino a este parlamento participó en la comisión de trabajo y justicia y nos contó que sufrió y sigue sufriendo violencia machista

consultas y asistencia letrada dosieres judiciales y también de los sistemas de control del infractor y nos narraba que estos sistemas de control han fallado porque el agresor

edo huts nabariak dituztelako ziortza nos contó cómo funciona mejor dicho cómo no funciona esa pulsera electrónica que se le impone al agresor ese sistema de control telemático de la ertzaintza que supuestamente detecta

radio de quinientos metros en este caso concreto de la orden de alejamiento del centro de control de la ertzaintza se le comunica a ziortza en numerosas ocasiones incluso varias veces en la misma madrugada que el localizador gps

presuntamente se coloca o se quita el dispositivo y depende de él que tenga batería o que por el contrario está este agotada parece que es voluntad del agresor reincidente estar localizable o no por el contrario

es saber dónde se coloca liza este porque su integridad física y su vida

sailburuok legebiltzarkideok egun on la violencia de género efectivamente es una realidad dramática para las víctimas también muy compleja desde el punto de vista de

y exige un procedimiento de ejecución bien definido y sostenido en el tiempo y con ese objetivo con ese objetivo claro evitar la reincidencia en el maltrato

a comisaria cuente con personal especializado y con procedimientos de actuación bien definidos y con procedimientos de respuesta perfectamente establecidos los casos de violencia de género y violencia doméstica en euskadi tienen a día de hoy un reflejo de cuatro mil novecientos doce expedientes en ejecución en la ertzaintza lo que afecta

y mil noventa y siete hombres la mayoría de ellos menores veintisiete

cincuenta y siete con vigilancia permanente es decir con escolta setenta y cuatro con servicios de contra vigilancia y novecientos cuarenta y dos víctimas disponen de teléfono bortxa el teléfono bortxa que es el servicio que el departamento y la ofrece a todas las víctimas como una herramienta útil de gestión de su seguridad ahora bien una aclaración las pulseras telemáticas no las asigna la ertzaintza sino que las asignas los jueces y las juezas y la gestiona el propio ministerio de justicia a través

las pulseras se incorporaron en dos mil nueve a los sistemas de protección a las víctimas con tres objetivos fundamentales hacer efectivo el derecho de la víctima a su seguridad documentar el posible quebrantamiento de las medidas de alejamiento y disuadir al agresor es cierto y no se puede negar que

pero también y lo he dicho en otras ocasiones no es menos cierto que tal y como han expresado no solamente las víctimas sino también las autoridades judiciales y la propia fiscalía se constatan deficiencias técnicas en el sistema que pueden llegar a generar revictimización en la personas protegidas la propia ertzaintza y este

en la ponencia en el senado solicitó que se exploraran nuevos desarrollos tecnológicos para minimizar el impacto que se está generando justizia ministeritzari

arzuaga jauna zurea da hitza bai eskerrik asko efectivamente nos da algunos datos sobre qué medidas se están

esperaba que usted nos dijera algo nuevo sobre estos mecanismos

qué pasa cuando no están funcionando o porque las víctimas tienen que en cierta manera asumir esa carga de que el sistema no esté funcionando en efecto son los jueces quienes deben de decidir las medidas cautelares que se imponen pero es que al juez se le puede ofrecer herramientas para que

decrete unas medidas cautelares u otras y si usted detecta que unas

entiendo que podrá proponer y proporcionar a los jueces otras medidas

y la imposición de un escolta y es precisamente estas medidas las que estamos demandando y que además sean medidas que impongan la carga no sobre la víctima sino precisamente agresor y espero que usted haga una valoración al respecto y que proponga algún tipo de sistema porque es que estas víctimas

esperar que esto falle principalmente porque en el caso de ziortza y nos dijo aquí

después se arrepienten precisamente porque ven que el sistema no funciona esto es un fracaso del sistema y espero que usted adopte la responsabilidad

le insisto señor arzuaga el sistema de las pulseras telemáticas no corresponden a la

efectivamente usted los conoce le he comentado hay un sistema intermedio que es el bortxa el teléfono bortxa de atención inmediata a estas

pulseras telemáticas corresponde al ministerio de justicia en el caso concreto del departamento y de la

innovación en el propio bortxa de hecho estamos configurando una alternativa al actual teléfono en una alternativa en formato app

y que ofrezcan un mayor nivel de discreción y sigan ofreciendo esos mecanismos eficaces de autoprotección eta nola nahi ere garbi utzi nahi

baloratua la valoración del servicio de atención a las víctimas en el caso de la ertzaintza después de las encuestas que se realizan una valoración alta concretamente de más de un nueve sobre diez por tanto como le digo tenemos medidas intermedias medidas que están ahí desde las preventivas

son medidas que se ofrecen y que estamos mejorándolas continuamente pero insisto

lehendakari consejeros compañeros jon darpón compañeros y compañeras parlamentarios

ya hablaremos después de navidades ahora solo le voy a preguntar por algunas cosillas respecto a la pasta el siete de marzo del dos mil trece el parlamento de gasteiz adopta un acuerdo a favor de la integración funcional estructural y orgánica del oncológico con el hospital de donostia y en la red pública osakidetza la parlamentaria

y la exparlamentaria del partido socialista blanca roncal ganan por chiripa treinta y seis treinta y cinco una votación

de que usted haga esa valoración funcional orgánica y estructural para la sostenibilidad financiera y el futuro del oncológico

no siempre a veces tenemos razón en el parlamento no siempre a veces tenemos razón y la mayoría

pero no ha hecho caso al parlamento el oncológico hoy vive escasamente con veintitrés millónes de euros anual que se hizo

treinta y tres es la propietaria ha habido

déficits importantes entre tres y cuatro millónes y algún

dice que va a la quiebra pero ha habido una serie de operaciones financieras y dentro del oncológico como un alien se ha montado una cosa que llaman

en el oncológico que no tiene nada que ver con el cáncer

no tiene nada que ver con la integración funcional del oncológico en la red pública pero ahí se ha montado no sabemos nada de su actividad financiera

los veintitrés millónes los beneficios de la actividad privada la variable y descendente participación económica de la obra social de la kutxa hoy en el oncológico

nos vamos a la quiebra qué hacemos señor consejero eskerrik asko uria jauna erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

pero efectivamente el plan oncológico de euskadi aborda el modelo de atención oncológica y la organización de los recursos del sistema sanitario de euskadi entre los que se encuentra

pero obviamente la financiación de onkologikoa no es el único aspecto ni tan siquiera el principal a abordar el citado plan de hecho el plan oncológico pretende ser más amplio y ambicioso para abarcar una atención oncológica integral situando en el centro de atención todas las necesidades

en la mejora del sistema sanitario en su conjunto para ofrecer a estas personas

como emocionales y a lo largo de todo el proceso oncológico y por supuesto

importante de nuestro sistema sanitario y como tal

eso mismo dijo en el dos mil trece zehatz mehatz exactamente eso mismo dijo aún más

sostenibilidad financiera pero no hizo caso al parlamento ni en el dos mil trece ni en el dos mil catorce

un mercado dentro del oncológico operaciones financieras que desconocemos no sería mal una auditoría financiera del oncológico

los médicos la dirección están bastante confundidos con esta situación no va a hacia un hospital de cáncer

el alquiler de quirófanos por qué no lo compran a las franquicias a las aseguradoras

que lo compren no pueden porque es muy difícil de sostener

en la red pública y solamente se sostiene financieramente políticamente y funcionalmente en la red pública pero de eso hablaremos después de navidad usted descanse

no creo que precisamente a trabajar sea usted la persona más adecuada para seguirme después de navidad

procure no coger mucho más peso el plan oncológico presenta cuatro ejes de actuación en primer lugar barkatu barkatu barkatu

en primer lugar plantea como seguir avanzando en la promoción de la salud y la prevención del cáncer por una parte

en los niveles local y comunitario y por otra fortaleciendo los programas

en segundo lugar plantea intervenciones para mejorar el modelo asistencial destacando en este ámbito el encaje onkologikoa y de la oncología del hospital universitario de donostia

en tercer lugar plantea intervenciones para mejorar los sistemas de información un elemento básico para avanzar tanto en la medición de resultados como en los costes de los mismos

y de la investigación en cáncer durante la pasada legislatura uria jauna se avanzó en la integración funcional en todos los servicios asistenciales de onkologikoa y del hospital universitario de donostia

que es que pague el gobierno cualquier tipo de centro

y en el resto de euskadi pero igual en esto sus políticas y las nuestras no coinciden

pero somos conscientes de que el objetivo más allá de una integración funcional es consolidar una oncología única para gipuzkoa dentro de un modelo de atención

diferentes escenarios que permitirán un modelo que respete la naturaleza de las instituciones implicadas proporcione un marco de financiación

y garantice una atención oncológica integral y de calidad
a todas las personas que viven en euskadi ese es el objetivo eskerrik asko darpón jauna eskerrik asko

y la principal organización internacional en el ámbito turístico su misión se dirige a la promoción de un turismo responsable sostenible y accesible además para todos en colaboración con las administraciones públicas de los estados miembros impulsa el turismo que contribuye al crecimiento a un desarrollo incluyente

e instrumentos de turismo sostenible y competitivo fomenta además la formación en materia de turismo y trabaja con el fin de hacer del turismo una herramienta eficaz para el desarrollo económico mediante proyectos de existencia técnica en más de cien países del mundo

defiende la aplicación del código ético mundial para el turismo con el fin de maximizar la contribución socio económica del sector

a la vez sus posibles efectos negativos y este organismo se ha comprometido a promover el turismo como un instrumento para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible encaminados a reducir la pobreza y a fomentar el desarrollo

y entre sus miembros figuran ciento cincuenta y ocho países seis miembros asociados y más de quinientos miembros afiliados que representan a diversos sectores y este organismo mundial del turismo tiene un consejo ejecutivo un órgano que toma decisiones de gran relevancia y proyección a nivel internacional y ese consejo ejecutivo se reúne por lo menos dos veces al año y lo hace de manera rotatoria en ciudades de todo el mundo pero también ciudades que se consideran ejemplares en ámbito de las buenas prácticas turísticas en informaciones periodísticas

podría celebrarse en euskadi concretamente que la ciudad de san sebastián podría ser la sede de la primera reunión de su consejo ejecutivo en el año dos mil dieciocho

que el gobierno vasco entre otras instituciones estaba teniendo un papel fundamental y pro activo en ese objetivo por eso señor consejero de turismo comercio y consumo

en relación a la posibilidad de que efectivamente donostia san sebastián sea la sede elegida para la próxima reunión del consejo ejecutivo de la organización mundial de turismo gracias

efectivamente la organización mundial del turismo es un organismo dependiente de naciones unidas fundada en mil novecientos setenta y cuatro y encargado en materia turística

de ciento cincuenta y ocho países un consejo ejecutivo

y una secretaria general que sería el órgano ejecutivo

la próxima reunión del consejo ejecutivo a euskadi que como ha dicho se reúne dos veces al año en los últimos años las reuniones se han celebrado en rovinj croacia en medellín en luxor en madrid o la última en septiembre en china españa es sede permanente de la organización mundial de turismo y por ello además de contar con un asiento

interviene en la designación de las sedes de las reuniones del consejo ejecutivo en junio de este año se dirigió al departamento así como a las autoridades turísticas de otras comunidades autónomas para ofrecer la posibilidad de

dos mil dieciocho que además será la primera a la que asistirá el nuevo secretario

pololikashvili elegido en la última asamblea general

tras distintos contactos y con algún contratiempo finalmente encauzamos la posibilidad de que efectivamente

en octubre además tuve ocasión de recibir el apoyo también

la mesa de dicho consejo ejecutivo han sido varios los contactos y las reuniones que desde mi departamento se han celebrado con representantes del ministerio cuyo apoyo además agradezco aquí

puedo confirmarle que efectivamente estamos en el buen camino de traer la próxima reunión del comité ejecutivo

las sesiones del consejo se desarrollarán en tres días el primer día se dedicará a la recepción de las delegaciones de los distintos países que acudan a la reunión

y el tercero a una sesión temática específica en la que podremos proponer el tema en tanto qué anfitriones y finalmente acabará con una declaración y conclusiones

es además una magnífica ocasión para mostrar euskadi y sus recursos turísticos a los mandatarios de turismo y además la presencia de mandatarios cuya gestión va más allá del turismo también ofrecerá la oportunidad de otros interesantes contactos de trabajo en otras áreas de gobierno el protocolo de colaboración establecerá las necesidades técnico logísticas

entre otros la elección efectivamente de san sebastián como la ciudad sede de la centésimo octava reunión del consejo ejecutivo de la omt

ciudad fue acogida de muy buen grado por parte de la delegación

y además es una ciudad que conoce el nuevo secretario general a partir del uno de enero de dos mil dieciocho

actos más importantes del turismo a nivel mundial se celebre en euskadi y podamos rentabilizar la buena imagen y la buena racha del sector de cara a la proyección

es además un evento organizado por y para instituciones públicas y por todo ello creo que podremos cuando finalmente cerremos el acuerdo legítimamente felicitarnos por lograr que este acto se celebre en euskadi estamos además por la repercusión internacional del evento en contacto con la oficina del lehendakari a quien informamos y con quien contamos para cerrar también

muy buenos días a todos señor lehendakari parece que todo le va muy bien tiene usted este año ya

también resuelto los problemas que teníamos respecto del cupo y eso se ha cerrado también este año su partido gobierna en todas las instituciones

es envidiable la posición que han ocupado e incluso al señor esteban le han dado el premio al mejor orador en el congreso de los diputados

lógicamente satisfecho yo como no soy envidioso me alegro de que las cosas le vayan bien a usted y que le vayan bien al gobierno y espero que eso se traduzca en que le vaya bien a euskadi pero eso tiene

tiene un problema tiene el problema de que se considere

yo le entiendo porque ustedes acumulan un espacio tan amplio de poder

se puede enfadar la derecha se puede enfadar la izquierda

moverse en alguna dirección puede perjudicar los intereses las ambiciones de algún colectivo entiendo que todo invita a no cambiar las cosas pero los retos de euskadi

y tenemos verdaderamente preocupaciones de cara al futuro creo que tiempo de estabilidad es un tiempo de reformas le manifiesto que nuestro apoyo a la acción del gobierno y a que pueda tener esa estabilidad consiste en eso estabilidad

a los problemas que tiene euskadi y algunas son inaplazables y creo que irán bien si usted las afronta de una manera determinada las afronta con liderazgo implicándose las afronta también desde el diálogo y las afronta una posición de insatisfacción de ambición

y de ver los riesgos del futuro hemos hablado de algunas en concreto de la necesidad de reformar una educación que está ofreciendo malos resultados

la mitad de los trabajadores jóvenes que teníamos hace quince años y que por tanto

o de la previsión también de la evolución demográfica en euskadi que hace que si no hacemos nada en diez años tendremos ciento ochenta mil personas menos trabajando de que los vascos somos muy solidarios

en el conjunto de españa y esto también es un dato bueno para los que se meten con el concierto se vienen a recaudar tres mil novecientos euros por habitante aquí se recaudan cinco mil novecientos euros por habitante pero una clase trabajadora

con sueldos menguantes no puede soportar una tensión de esa naturaleza a futuro por tanto es necesario afrontar cambios reformas de calado reformas que implican también un riesgo político que implican que usted saque lo mejor de sí mismo

con valentía y con ambición y corriendo ciertamente un cierto riesgo político yo espero que usted nos pueda contar cómo las va afrontar le pido ese liderazgo fíjese

porque en la primera fase no daba respuesta al problema de competitividad de nuestras empresas

usted se implicó la hemos podido cambiar las próximas no las podemos afrontar así

con ese liderazgo y esas ganas de colaboración va a terminar el año aprobaremos los presupuestos tenemos un calendario de mucho trabajo por delante tenemos disposición a trabajar yo también le había como le he dicho

hasta la vuelta deseo que las pase muy felices pero que piense en el trabajo duro

sailburuok jaun andreok egun on en definitiva señor alonso me pregunta usted con qué criterios abordo el plan de reformas que necesita euskadi

estrategia compartida transparencia y sostenibilidad y todo ello redundará además en lo que pueda ser un concepto que estamos intentando que sirva para la implicación de todos los grupos parlamentarios también que es auzolana

así como las asociaciones o entidades de referencia en cada ámbito transparencia porque todas las propuestas de reforma han sido presentadas en este parlamento y se encuentran abiertas a incorporar las aportaciones de los grupos y sostenibilidad las reformas se han analizado con realismo y rigor con una óptica de medio plazo asumiendo los compromisos que podemos mantener con los recursos que disponemos

doce planes estratégicos vigentes y los otros tres los haremos este mismo mes y además

de nuestro programa legislativo mire destaco algunas propuestas de reforma plan de empleo basque industry cuatro punto cero

plan de gobernanza e innovación pública proyecto de ley de puertos y transporte marítimo patrimonio cultural o sostenibilidad energética propuestas de reforma de lanbide

informe de transferencias pendientes cuenta usted por lo tanto con material más que suficiente para plantear también sus aportaciones concretas a las propuestas de reformas que el gobierno plantea y que yo lidero empleo industria familia emprendimiento convivencia vivienda autogobierno educación e i te be lanbide reformas recogidas en nuestro programa de gobierno en solo un año

en todos los ámbitos concretas y compartidas presentadas de forma transparente con la vocación de mejorar la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía hoy efectivamente señor alonso es el último pleno de control llegan

las bases y las orientaciones se presentaron en abril de este año

el texto articulado de la reforma de la ley que se remitirá al parlamento en dos mil dieciocho según el calendario previsto y si la tramitación

también en el liderazgo en relación a lanbide se está trabajando en el seno del consejo de administración un documento sobre mejoras modernización y reforma de la gestión y el documento definitivo se presentará en la comisión parlamentaria en febrero de dos mil dieciocho en sesión monográfica y con posibilidad también de propuestas de resolución por lo tanto señor alonso yo también le traslado mis mejores deseos y le pido una reflexión para el año dos mil dieciocho y es reformar también su criterio y sumarse a la ponencia de convivencia y derechos humanos señor alonso urte berriaren

politika publikoa decía que el estilo de vida y el modelo de crecimiento económico que tenemos los países desarrollados se sostiene gracias también al uso de recursos pertenecientes a otros países creo que tenemos que ser responsables detenernos a pensar en el impacto que tiene en dicho modelo

del mundo en este sentido la internacionalización o la globalización de la economía hace que países desarrollados deban asumir su responsabilidad también de los impactos que generan a escala global existe por tanto un intercambio desigual entre las poblaciones enriquecidas y las empobrecidas porque euskadi no es ajeno nuestra huella ecológica indica que necesitaríamos un territorio unas siete veces mayor para mantener nuestro nivel de vida con recursos propios lo que provoca por tanto un elevado déficit ecológico que proyectamos hacía terceros países hacia el conjunto del planeta

al documento de orientación generales de cooperación plantearemos una apuesta por la dimensión política de la cooperación

crítica que genere propuestas alternativas de desarrollo que genere movilización social y que genere o que tenga la coherencia de políticas como una de sus prioridades

que sea una política consolidada y estable una política no sujeta a intereses concretos sino que se sustente en el cumplimiento de la propia ley y del diálogo entre todas las partes

ante el debate que se está teniendo en los agentes de cooperación fuertemente además por

la introducción de sujetos mercantiles de empresas vaya en la planificación y en la acción de la

que tienen que desarrollar esta política pensamos que el actual modelo de relaciones comerciales de momento impide que esta cooperación que podrían hacer las empresas con dinero público

permítanme la licencia limpia las relaciones

de internacionalización con estos criterios no hay garantía de que esto se haga así por eso y sabemos que somos muy pesados con esto y cito un documento de su gobierno sobre las ponencias de políticas

deben promover al mismo tiempo una adecuada inserción de euskadi en la economía global y la defensa de un marco de convivencia basado en los derechos de las personas y la conservación de los recursos para las futuras generaciones

poner la coherencia de políticas para el desarrollo en el centro de las preocupaciones a la hora de elaborar las políticas

elorza también a la señora tapia que en el actual proceso de revisión de la estrategia

de internacionalización es imprescindible que se introduzcan estos elementos con criterios evaluables con criterios transparentes

coherencia de políticas y repetimos y lo he dicho aquí varias veces que no buscamos criminalizar la acción empresarial pero la realidad

de la actividad comercial exterior sobre todo si tiene apoyo público para evitar posibles deficiencias y para proyectar también que también creo que es interés de todos y todas mejor la imagen de euskadi

pero señor lehendakari además de todo esto la solidaridad y la cooperación también se hace con cifras no lo digo yo también lo dice la propia política de su gobierno que es verdad que tiene un

a ese cero coma siete que establece la ley del dos mil siete de cooperación al desarrollo

la cooperación al desarrollo del gobierno vasco supuso un cero coma cuarenta y nueve por ciento del presupuesto cincuenta millónes de euros y lamentablemente en el año dos mil trece sufrimos el mayor recorte que se bajó a veintiuno millónes y aproximadamente un cero coma veintitrés por ciento en dos mil catorce aprobó este parlamento un documento de orientaciones generales del tercero

en un documento en estudios económicos del propio gobierno de unas orientaciones que se decía unas orientaciones que además

hicieron un esfuerzo de entender la situación en la que

en aquel momento y se aceptaron aquellas orientaciones más o menos en dos mil catorce se establecían treinta y cinco millónes un cero coma treinta y cuatro que tenía que ir

a la cooperación insisto según los propios números y los informes y las memorias económicas del gobierno pero la realidad es que solo dos años después en el año dos mil dieciséis se produjo el primer incumplimiento de dichas orientaciones porque donde decía cincuenta dijo cuarenta y tres en el año dos mil diecisiete donde decía cincuenta y cinco volvió a decir cuarenta y tres incluso

euros menos que en el año anterior y en el dos mil dieciocho

millónes cuatro millónes menos que lo aprobado por este parlamento para dos mil dieciséis y si lo comparamos con lo que estaba en esas orientaciones generales para el año dos mil diecisiete serían nueve millónes de euros ahora mismo se presenta una nueva

pero señor lehendakari permítame que le diga que no podemos confiar en estas nuevas orientaciones porque las anteriores que ya eran de rebaja sobra la propia ley de cooperación que es una ley que vuelvo a decir que tiene consenso país en este parlamento y en la parte social ya

realmente baja o conservadora que no es complicado cumplir de hecho en este año según el nuevo planteamiento de orientaciones estaría cumplida pero nada nos permite confiar en que para dos mil veinte o para dos mil veintiuno

que esto sea así pero también es verdad que muy lejos del cero coma siete por ciento porque esperamos que la economía

se redistribuya pero ese compromiso también porcentualmente quedaría lejos del cero coma siete bi mila

es el momento de pasar de las palabras a los hechos los presupuestos dos mil dieciocho creo que son una ocasión perdida bueno todavía vamos a tener ocasión la semana que viene

tenga un nuevo impulso pero bueno seguiremos intentándolo con esta interpelación con esta moción con las propuestas que haremos a las orientaciones generales

para hacerlo por eso lehendakari le interpelaba

porque pensamos que es hora de plasmar esos compromisos esa ley ese consenso social que hay en euskadi
en los presupuestos públicos de todos y de todas eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna erantzuteko lehendakari jauna

planteamenduagatik su interpelación señor martínez tiene que ver con un texto

que puso en valor los sentimientos de solidaridad de la sociedad vasca y yo lo comparto un texto ambicioso que conforma un sistema integral y con matices propios que considero merece una valoración positiva en su conjunto y yo lo hago también muy especialmente si asumimos con realismo y rigor

y cuál es la situación actual yo así lo creo necesario porque señor martínez compartiendo plenamente sus preocupaciones además

hemos tenido y tenemos que mirarnos hacia dentro también y hemos tenido y tenemos que ocuparnos también desde dentro y si usted pretende hacer abstracción de esta realidad se olvida

pues va a ser muy difícil que avancemos aun cuando compartamos

le digo en cualquier caso y dado que su interpelación parece interesarse exclusivamente por una cifra numérica

al compromiso de solidaridad del gobierno primero incluso en los momentos más duros de la crisis económica hemos mantenido el compromiso con la cooperación muy por encima de los parámetros de nuestro entorno segundo el último lustro

tercero el compromiso se ha extendido tanto dentro del propio gobierno a todos los departamentos como al conjunto del ámbito institucional de euskadi cuarto las previsiones presupuestarias estrictamente asignadas a la ejecución de las acciones de cooperación competencia de la agencia vasca de cooperación para el desarrollo después de la necesaria minoración observada en el ejercicio dos mil trece

hemos cumplido todos los compromisos no me citará usted ni uno solo de los proyectos que no haya contado con nuestro respaldo y a partir de dos mil trece

no es ningún secreto señor martínez es de conocimiento público que la aprobación de la ley tuvo lugar como he dicho antes en el año dos mil siete

y no es ningún secreto la situación de crisis económica que se desencadenó a partir del año dos mil ocho una crisis que ha afectado a todo el mundo una crisis de la que todavía

y ocuparnos también de lo de dentro una crisis económica profunda y permanente que en el año dos mil doce situaba en recesión en el año dos mil doce solamente hace cinco años una crisis que obligó al gobierno vasco a reducir el presupuesto del año dos mil trece como he dicho en ocasiones anteriores en mil cien millónes de euros y le recuerdo

una crisis que obligó a adoptar medidas drásticas para salvar lo esencial

todos los programas del gobierno tuvieron que ajustarse a esta realidad y este esfuerzo no lo hizo solo el gobierno lo hicieron las familias las empresas los comercios las personas afectadas las personas profesionales y autónomas este esfuerzo tengo que reconocerlo como lehendakari lo hicieron también

y gracias a aquel esfuerzo hemos podido recuperar las inversiones año a año mantener todos los proyectos en marcha y abrir cada ejercicio nuevas ocasiones económicas nuevos proyectos destinando más recursos presupuestarios

ido aumentando las dotaciones de la agencia vasca de cooperación para el desarrollo y esto es lo importante

y hemos ido extendiendo la cooperación tanto al conjunto institucional de euskadi como en el seno de los departamentos de nuestro propio gobierno afortunadamente hoy en euskadi el compromiso con la cooperación se ha traducido en un compromiso con

así las previsiones presupuestarias para la cooperación no son de manera exclusiva las recogidas en el presupuesto de la agencia que dicho sea de paso para este año dos mil diecisiete eran de cuarenta y tres millónes en el proyecto de presupuestos del año pasado más dos millónes presentada por el grupo popular total cuarenta y cinco millónes que en el proyecto de presupuestos presentado para el ejercicio dos mil dieciocho

pero insisto que no son solamente de manera exclusiva las recogidas en el presupuesto de la agencia las previsiones presupuestarias para la cooperación hay más acciones que se ejecutan con fondos procedentes de otros órganos de la propia administración y esta es una nueva realidad y le detallo

solo a este año dos mil diecisiete secretaría general de acción exterior caravana vasca con el sahara para garantizar la seguridad alimentaria en los campos de personas refugiadas

secretaría general de derechos humanos convivencia y cooperación respuesta humanitaria a la crisis que sufren las personas refugiadas en las fronteras europeas inversión

departamentos de educación y cultura y política lingüística asistencia técnica a través de la universidad pública

departamento de educación también subvención a la universidad pública para la concepción de becas y ayudas de estudio en cooperación internacional descentralizada

departamento de empleo y políticas sociales en programa de juventud vasca cooperante con el objetivo de sensibilizar a la juventud de euskadi y fomentar una cultura de solidaridad

e intervenciones quirúrgicas realizadas a menores procedentes de países empobrecidos o inmersos en conflictos y asistencia sanitaria a menores en acogida temporal

departamento de desarrollo económico e infraestructuras apoyo al foro rural mundial en el marco de la promoción de la agricultura familiar a través de la cooperación

emakunde ayuda al fondo de población de las naciones unidas para la participación del programa sobre servicios esenciales para mujeres y niñas sometidas a violencia

ura agencia vasca del agua aportación del cinco por ciento de lo recaudado en concepto de canon del agua a proyectos de cooperación que gestiona la agencia vasca de cooperación para el desarrollo inversión ciento veintiuno mil euros y así podrimos citar otros casos más

un camino ha extendido un compromiso y esta vía abre una nueva cultura de cooperación para el desarrollo en la que debemos profundizar y que vamos a seguir recorriendo he reconocido que la ley de cooperación fue aprobada en un momento en el que las directrices del ámbito internacional establecían determinados parámetros de actuación hoy miramos al futuro la próxima semana como usted decía se va a debatir en este parlamento el documento de orientaciones de la planificación estratégica con carácter previo a la aprobación del plan director dos mil dieciocho dos mil veintiuno asumimos en el gobierno que es necesario realizar un balance de estos últimos años y abordar un debate que sin renunciar a las titularidades de la cooperación vasca permita su adaptación

a la que usted también hacía referencia y estas nuevas orientaciones de las políticas de cooperación y la posibilidad de acometer las reformas que sean precisas

en el nuevo plan director que deberá cumplir los mandatos contenidos en las orientaciones generales en la planificación estratégica por lo tanto señor

a nuevos planteamientos de formas de modelos de objetivos

persiguen adecuar la acción política a las actuales realidades y necesidades del mundo globalizado presentar y compartir este plan director es una iniciativa del gobierno la mejor prueba de un compromiso de solidaridad que no es sino el reflejo del compromiso del conjunto de la sociedad vasca que compartimos obviamente

en las líneas generales probablemente estemos cerca o de acuerdo pero sí que es verdad que las

que ha señalado usted en el año dos mil diecisiete estaba previsto tener un presupuesto en las orientaciones generales actuales en las que están aprobadas hasta este momento de cincuenta y cinco millónes todavía incluso con todo eso estaríamos muy lejos que en ningún momento

en euskadi tanto personal que he sido parte de ella como grupo político la parte presupuestaria que hacemos es porque es que

que reconocemos que sufrimos todos los vascos y las vascas de crisis económica y de recortes que evidentemente también nosotros nos enfrentamos a qué tipo de recorte se podían hacer

la ley vasca de cooperación es un porcentaje es un cero coma siete por ciento del presupuesto y en este momento estamos muy lejos de ese compromiso y sí que es verdad

y económico muy determinado pero lo que se establece en la ley es exclusivamente el cero coma siete por ciento del presupuesto de en este caso la comunidad autónoma vasca porque la reducción presupuestaria tiene efectos evidentemente

no solo con el dinero del gobierno vasco sino de todas las administraciones vascas bajo un treinta y cinco coma cinco por ciento en el número de proyectos un veinticinco por ciento y se abandonaron

zonas geográficas y bastantes países en los que hasta ese momento era prioritaria la política de cooperación

vascas porque la política pública de cooperación garantiza como decía en la primera intervención el cumplimiento de derechos de miles de personas

por lo menos mitigar los efectos de este sistema económico que nosotros evidentemente criticamos y pensamos y seguimos reivindicando que hay que reconocer la política pública de cooperación

de declaración en la parte de reconocimiento en la parte de reconocimiento teórico

me valdría no tener orientaciones generales si hubiera un compromiso de que año a año el cero coma siete por ciento del presupuesto se dedica a cooperación podría ser otra opción a trabajar si por ejemplo igual que con la caravana vasca con el sahara firmamos todos los grupos políticos

una política de consenso como es la ley de que ese cero coma siete lo reserváramos siempre que fuéramos flexibles quizás en la ejecución pero que ese cero coma siete fuera siempre

o que había en el año dos mil trece ni la situación interna del país de ese recorte que hubo pero quizás la diferencia más grande que tengamos entre la intervención que ha tenido usted y las opiniones que estamos emitiendo nosotros

cooperación la política pública de cooperación también aquí en euskadi es una política interna otra cosa es que también tenga y una parte fundamental tenga efectos en el exterior porque mucho presupuesto se dedica al exterior pero como decía la propia ley en las propias orientaciones generales se habla de un principio de solidaridad básica aquí en euskadi con el conjunto del mundo se hacen nuevas críticas evidentemente más suaves de las que podemos desde elkarrekin podemos al actual sistema económico que

en el planeta pero que esa política busca el mismo objetivo que tenemos nosotros nosotros vamos más hacía la transformación

en ese sentido pero por lo menos van a mitigar los efectos que de una manera limitada también es verdad euskadi hace en el exterior

aun así es importante que nos lo tomemos como una política interna no solo por los proyectos que se hacen aquí también de educación para la ciudadanía educación para

que ha mencionado en su última intervención pero también por la propia

se desarrollan allí y que también es una imagen y una

la proyección de la imagen de euskadi al exterior que debería ser y en nuestra ocasión y nuestras propuestas están ahí porque somos muy pesados en hacer propuestas en ese sentido en la

me anima el que viendo que en las líneas generales como usted decía podíamos estar o podemos estar bastante próximos o incluso hasta

lo que plantea es la discrepancia en las líneas presupuestarias yo creo que en todo caso

con realismo con rigor en su contexto y en relación a nuestro entorno

y yo querría insistir en decir que euskadi es la comunidad más solidaria de todas las comunidades del estado

más de un tercio de todos los recursos económicos que todas las comunidades destinan a cooperación para el desarrollo y creo que esto es necesario subrayarlo qué podemos hacer más sí lo estamos haciendo creo que también lo hacemos porque no nos conformamos y yo tampoco me conformo pero nuestro compromiso sigue vigente y con los pies en la tierra

del gobierno y desde todas las instituciones vascas no solamente los contemplados en la agencia vasca de cooperación al desarrollo he indicado que hay acciones políticas en el ámbito de la cooperación para el desarrollo que se ejecutan por órganos de la administración general e institucional ajenos a la agencia vasca de cooperación con cargo a sus propios presupuestos beraz martínez jauna

permítame para terminar ofrecerle también tres datos de contexto son datos objetivos que pueden servirnos como referencia para interpretar para entender y para dimensionar adecuadamente el compromiso

y el compromiso demostrado por el conjunto de la sociedad vasca y creo que si bien la ley dice lo que dice efectivamente creo que también tenemos que ser conscientes del contexto y apelaré a ello permanentemente en relación a lo que es la realidad y el principio de realismo y de rigor fíjese el ayuntamiento de zaragoza según su anteproyecto de presupuestos destinará a cooperación

un cero coma cuarenta y uno por ciento también el ayuntamiento de madrid ha destinado a cooperación en dos mil diecisiete

esto es un cero coma veintidós por ciento del presupuesto consolidado

tiene en dos mil dieciocho un presupuesto para cooperación de veintidós millónes seiscientos mil es decir un cero coma diez por ciento

ha hecho está haciendo y va a seguir haciendo un esfuerzo en materia de cooperación que debe ser mejorado sin duda que debe ser ampliado y reforzado sin duda

y creo que es un esfuerzo que merece respeto y reconocimiento y sabe por qué señor martínez

tenemos constancia de que respetan y reconocen las políticas de cooperación que desarrollamos en euskadi

buenos días dos mil diecisiete ha sido un año

ochenta años de muchos terribles acontecimientos el recuerdo de las víctimas es algo que vamos a defender siempre en el futuro

y de los crímenes cometidos en la guerra civil eso nos une

mayoría como nos une a muchos la memoria de las víctimas del terrorismo

con gran significado con un gran sentido de la injusticia que supone una guerra

en la inauguración del columbario en elgoibar en enero del dos mil diecisiete en el recuerdo de los fusilamientos de azazeta en el bombardeo de durango

gogora con los fusilamientos de santoña recordando a las víctimas los homenajes por ejemplo el de lauaxeta otros actos en homenaje a los niños y niñas de la guerra civil

exhumaciones que han existido de restos de excombatientes

actos y homenajes como estos han tenido un recuerdo con referencias muy destacadas

y siempre lo recordaremos sin embargo desde las instituciones que han organizado estos actos gobierno vasco gogora

no se han organizado actos para recordar entre otros crímenes la matanza de las cárceles de bilbao ocurrida hace casi ochenta y uno años

otros crímenes como los crímenes y las matanzas de los barcos prisión cabo quilates o altuna mendi o los fusilamiento de los cementerios de durango o de derio o los fusilamientos del mayor crimen de civiles que hubo en álava en elosu es decir

lo que usted hizo el año pasado el tres de diciembre

las redes sociales el larrinaga ochenta urte donde reconocía la injusticia que padecieron

asesinadas el cuatro de enero del treinta y siete en bilbao en las cárceles pero yo creo que es necesario señor lehendakari un paso más implicando a la sociedad en ese recuerdo implicando a la sociedad en el recuerdo como lo hemos vivido en otros recuerdos en los que le

esas injusticias muchos descendientes echan de menos gestos de memoria y reconocimiento nos lo han trasladado y yo le quiero decir señor lehendakari qué intención tiene

larrinaga o el cementerio de derio o de durango o

eskerrik asko legebiltzar buru andrea señor barrio sabe usted que el gobierno vasco

de la guerra civil lo hemos hecho siguiendo el criterio de la ley de memoria histórica del año dos mil siete y cito su artículo dos punto uno que dice textualmente

se reconoce y declara el carácter radicalmente injusto de todas las condenas sanciones y cualesquiera formas de violencia personal producidas por razones políticas ideológicas o de creencia religiosa durante la guerra civil así como las sufridas por las mismas causas durante la dictadura

al reconocer a las víctimas de esas injusticias prueba de ello como usted bien ha dicho y que además me costó

luego explicada por parte de su compañero de bancada en este momento en aquel momento es la declaración que yo realicé creo que fue si no recuerdo mal no el tres de diciembre del año pasado sino el cuatro de enero

con motivo del ochenta aniversario de los doscientos veinticuatro asesinatos cometidos en las cárceles de bilbao a los que usted hace referencia a los barcos cárceles también a los cementerios y en el propio lehendakari agirre y esto es importante decirlo porque hay que situarlo también en su contexto el propio lehendakari agirre ya así lo hizo también en aquel momento

que daremos a conocer en breve con los datos nominativos de todas las personas fallecidas durante la guerra civil

insisto en que ya el propio lehendakari cosa que en otros casos no se podría decir lo mismo el propio lehendakari aguirre hizo también en relación

a un plan organizado que daba continuidad a una sublevación contra la democracia fue una estrategia de estado

y no hay equiparación posible para terminar yo valoro

la participación de todas las formaciones políticas en los actos de reconocimiento que hemos organizado su grupo y usted particularmente también lo ha hecho y otorgo gran valor a la unidad demostrada

es nuestro mejor homenaje a las víctimas y lo vamos a seguir haciendo eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna barrio jauna zurea da hitza

de la guerra civil pero yo sí que le pido que haga algo más por esas otras víctimas yo le pido que haga algo más las matanzas acabaron con la vida de abogados de bilbao de las arenas de getxo de elorrio y de san sebastián médicos viajantes estudiantes jornaleros empleados amas de casa

barberos confiteros institutrices relojeros tratantes pescadores funcionarios administrativos representantes armeros electricistas maestros sacerdotes frailes seminaristas albañiles barrenderos farmacéuticos además de militares y de policías

en los barcos en los cementerios señor lehendakari hay que hacer algo para implicar a la sociedad de la misma manera que lo hemos hecho durante este año dos mil diecisiete

pero hay que hacer algo estas víctimas necesitan y merecen un recuerdo también
desde las instituciones públicas como la que usted preside muchas gracias eskerrik asko barrio jauna lehendakari jauna erantzuteko

eskerrik asko legebiltzar buru andrea señor barrio sabe usted que el plan

recoge el objetivo de realizar un acto de reconocimiento general y nominal

la base de datos de todas las personas fallecidas en la guerra civil de todas durante ochenta años muchas de las víctimas de aquel periodo no han tenido apenas reconocimiento y muchas

la democracia tiene una deuda pendiente que las instituciones vascas sentimos como propia y vamos a tratar de saldar para sanar heridas y construir una convivencia conciliada con todas con todas las víctimas pero esta deuda también la tienen las instituciones del estado

el gobierno español cumpla con el mandato parlamentario que establece la ley de memoria histórica es un paso pendiente es un paso necesario y es un paso

vivimos en el mejor de los mundos posibles o eso es lo que nos decían los teóricos los ideólogos neoliberales hasta la llegada del

y a pesar de los estragos que esa crisis ha dejado en las condiciones de vida de millónes de personas en todo el mundo y de miles de personas aquí en euskadi muchas de las mentiras

siguen dominando el pensamiento de algunos círculos políticos

y de los medios de comunicación de masas que en una gran mayoría reflejan sus intereses una

y a los agentes económicos privados llegar a nuevos nichos de mercado relacionados con todo tipo de servicios públicos y de interés general bajo argumentos normalmente de eficacia de economía de especialización e incluso de competitividad sobre estos fundamentos ideológicos

ha sido asumida y practicada en las últimas décadas por diferentes administraciones públicas también por las administraciones en euskadi es un hecho probado en todas las latitudes que la privatización y las externalizaciones de servicios públicos solo acarrean degradación de calidad y peores condiciones laborales eso sí garantizando a gestores privados

la unión europea está utilizando todos los instrumentos políticos sobre todo

de la organización mundial de comercio para ahondar en la atendencia a adelgazar servicios públicos con el propósito de beneficiar sectores privados nosotros por el contrario constatamos que en nuestra sociedad aquí en euskadi el argumentario que justifica privatizaciones y externalizaciones es rechazado por falso por la mayoría de la gente y de manera especial es rechazado

nosotros consideramos que los servicios públicos son indispensables para una vida digna y sobre todo como herramienta necesaria de lucha contra la desigualdad el acceso a ellos es en nuestra opinión

y tiene que estar gestionado por ello públicamente como garantía básica y elemental para su consolidación es una obligación

la que nos pertenece a todos y que por lo tanto no debería delegar tareas propias en empresas que no responden a más criterios que el objetivo de obtención de beneficios de sus propietarios particulares en la actualidad existen dos métodos principalmente para realizar ese adelgazamiento del sector público en favor de sectores privados

donde tampoco en euskadi somos una excepción habría que recordar los casos de euskaltel o kutxabank por ejemplo y en segundo lugar las externalizaciones la gestión privada de tareas propias del sector público mediante concesiones públicas contratos conciertos sobre estas últimas es sobre las que nos gustaría conocer hoy los planes y planteamientos de su gobierno a futuro queremos conocer esto por dos razones principales en primer lugar porque esta administración como otras utiliza de manera regular este método del que se benefician algunas empresas

y que tiene como decía consecuencias en tres elementos calidad de los servicios

y la calidad de los empleos afectados y en segundo lugar porque hay una preocupación desde hace años por parte de las y los trabajadores públicos sobre el exceso de externalizaciones y sobre cómo esto afecta a la falta del empleo y a la calidad propiamente dicha

esa preocupación por la deriva externalizadora fue llevada por las centrales sindicales de nuestro país a la mesa general de la administración de la comunidad autónoma como usted bien sabe

a través del decreto ochenta y tres barra dos mil diez que usted también conoce perfectamente en dicho decreto se recogía todo un capítulo completo precisamente dedicado a las externalizaciones planteado por los sindicatos precisamente ante la necesidad de paralizar y revertir la tendencia hacia la externalización de servicios ese era también el espíritu de aquel acuerdo

atenderá preferentemente con medios propios los servicios que precise para el desarrollo de su actividad para nosotros la redacción no deja lugar a dudas

es atender con medios propios los servicios que precisa para el desarrollo de su actividad atender con medios propios y solo cuando esto no sea posible de ninguna manera se puede recurrir a servicios externos a servicios privados

la administración pública vasca debe atender con medios propios los servicios que precisa para todo el desarrollo de su actividad desde el inicio de la vigencia del citado acuerdo la administración asumía además el compromiso de no externalizar ninguna nueva actividad ni actividad existente que en ese momento no estuviese ya subcontratada en el periodo de dos mil diez a diciembre de dos mil diecisiete nosotros preguntamos no se ha externalizado nada

nos interesa saber cuáles son los planteamientos del gobierno de cara al futuro está dispuesto este gobierno a tomar las medidas necesarias para que la administración pública vasca

los servicios que precisa para el desarrollo de su actividad esto es lo que nos interesa saber hoy la intención de este gobierno sobre cómo gestionar la administración y los servicios públicos si mediante un modelo basado en medios propios o mediante un modelo mixto a través de medios propios y empresas privadas nos interesa sobre todo conocer hoy esto por parte de su gobierno más allá incluso de la discusión sobre el incumplimiento de los acuerdos de dos mil diez

y nosotros sostenemos que no no solo nosotros sabe usted que la totalidad de los sindicatos de nuestro país están denunciando que no se cumplen los acuerdos sobre no externalizar a mí me parece difícil que tantos colectivos diferentes nos hayamos puesto de acuerdo o nos estemos inventando una misma cosa a la vez

o no de aquellos acuerdos aunque sí me referiré a uno en concreto el acuerdo para constituir una comisión de seguimiento de las externalizaciones de servicios

y comisiones sectoriales los sindicatos han solicitado la creación de estas comisiones en reiteradas ocasiones sin encontrar respuesta por parte del gobierno

y los sindicatos sostienen que no se cumplen por qué razón no convocan a los sindicatos para constituir estas comisiones a qué tienen miedo en nuestra opinión

en contra de los criterios que dieron lugar a aquellos acuerdos pensados precisamente para paralizar y revertir la política externalizadora en nuestra opinión no se puede defender una buena administración pública y defender la subcontratación de categorías profesionales como cocina lavandería limpieza mantenimiento archivos informática fisioterapeutas

como labores de gestión recaudatoria operaciones estadísticas del eustat servicios sanitarios ambulancias servicios de emergencia

etcétera porque además luego pasan cosas como las que estamos conociendo estos días que parece ser que la empresa adjudicataria hace poco más de un mes de la seguridad de las dependencias de la ertzaina en oiartzun

acaba de entrar a trabajar con la administración y ya han empezado con retrasos en los pagos a pesar de haberse comprometido en dos mil diez a no externalizar ningún servicio más

el gobierno vasco sigue externalizando limpieza seguridad servicios informáticos orientación laboral atención telefónica encuestación traducciones etcétera señor erkoreka existe en este país una especie de administración paralela gracias a la política de subcontratación y externalizaciones

siendo además falso que con la externalización se ahorre dinero

por ejemplo a través del ahorro de impuestos sin ir más lejos que se ahorrarían con la contratación directa se podrían mejorar las condiciones de trabajo de los empleados y empleadas

permite además tirar los precios a las empresas privadas y eso abona aún más ese campo de cultivo para las externalizaciones de servicios públicos

acaba cayendo la calidad de prestaciones esenciales para la ciudadanía por eso a nosotros nos gustaría saber como ya le digo más que discutir una vez más sobre el cumplimiento o no de aquellos acuerdos nos gustaría saber la opinión

al futuro en cuanto a la gestión de la administración pública de toda la administración pública saber qué criterios son los que van a regir
en la administración pública en los próximos años muchas gracias eskerrik asko hernández jauna erantzuteko erkoreka jauna zurea da hitza

haciendo abstracción ahora creo que no sería de interés hacer otra cosa de las consideraciones de carácter

al inicio de su intervención a propósito del fantasma del neoliberalismo que recorre europa y

aplicándose de manera implacable a sus administraciones

podrían dar un debate ideológico interesante que no es lugar de acometer ahora permítame dar inicio a mi intervención con unas precisiones terminológicas que creo yo que son convenientes no por productos académicos que están absolutamente de sobra en un foro parlamentario como este sino porque estoy absolutamente convencido

no se puede llevar a cabo si no utilizamos todos por lo menos una cierta una mínima homogeneidad conceptual por tanto

no tanto en los conceptos pero sí después en la utilización de ejemplos ha deparado un tratamiento idéntico a situaciones enormemente distintas desde el punto de vista de su caracterización conceptual y desde el punto de vista también del tratamiento jurídico que ha de dárselas por tanto permítame iniciar

entre la privatización y la externalización

de ambas expresiones privatizar es que la administración pública o que el sector público renuncie a la titularidad de un servicio público

externalizar un servicio público es que reteniéndolo en manos públicas reteniendo su titularidad en manos públicas su gestión es encomendada a una empresa privada por las razones que sean de eficacia eficiencia por las razones que sean pero

es importante también distinguir entre la externalización

pero hay que distinguir entre la externalización y la no internalización

que asumir directamente servicios que ya están externalizados porque a veces se habla de externalizar en relación con servicios que llevan mucho tiempo externalizados

no internalizar sé que la expresión internalizar no está en el diccionario de la real academia de la lengua española pero permítame a efectos de

utilizarla en este caso por tanto hechas estas precisiones conceptuales bien pues yo me gustaría iniciar mi discurso con una con una afirmación de principio

yo niego que el sector público autonómico vasco o si prefiere el gobierno vasco

de externalización sistemática de sus servicios públicos

mucho menos aún de privatización sistemática de los servicios públicos en absoluto esto yo creo que se puede negar rotundamente usted es cierto que ha afirmado me ha parecido entender en su intervención que entre el año dos mil diez que cita como fecha en la que se adoptó el acuerdo de mesa general y el año dos mil diecisiete no se han producido externalizaciones pero me ha preguntado por el criterio que mantendrá el gobierno por tanto bueno en esto parece que coincido con usted que entre el dos mil diez y el dos mil diecisiete externalizaciones no se han producido y privatizaciones menos menos otra cosa es que pueda haber discrepancias entre la administración y la representación sindical en torno a la interpretación

esto puede existir pero existe en todas las organizaciones en las que existe una negociación colectiva se produce exactamente igual esa discrepancia y para eso hay mecanismos en los propios acuerdos de condiciones de trabajo para ir resolviendo las diferencias acordando las interpretaciones y encauzando las diferencias que pueden existir en torno al alcance y contenido de las expresiones bien

no puede más que seguir gestionando el marco vigente en la materia que viene marcado por tres referencias primera referencia la legislación de contratos del sector público insoslayable está vigente ahí

toda la actuación contractual del sector público la ley es

hay una nueva ley aprobada en cortes generales que entrara en vigor en marzo del año que viene y por tanto la primera referencia es esa ley de contratos del sector público ahora

la ley recientemente aprobada por cortes generales esa ley

los acuerdos de condiciones de trabajo suscritos por el gobierno con la representación sindical

al personal funcionario de la administración general exclusivamente yo creo que es más oportuno de cara a su interpelación corríjame si me equivoco pero creo que es más oportuno hacer referencia al acuerdo de dieciocho de noviembre del año dos mil nueve que se adoptó en mesa general

no solamente a los funcionarios de la administración general que son una mínima parte del conjunto del personal que trabaja en el sector público autonómico vasco por tanto primero la legislación de contratos del sector público en segundo lugar

y al planteamiento general del sector público autonómico vasco

y en tercer lugar el acuerdo adoptado en el seno del consejo de gobierno en desarrollo precisamente de las previsiones de ese acuerdo de condiciones de trabajo

de dos mil catorce en que se fijan las instrucciones sobre buenas prácticas en la contratación

bueno qué es lo que dicen estas previsiones usted ha hecho una lectura determinada efectivamente del acuerdo de condiciones de trabajo de la mesa general dice que hace una apuesta exclusiva

el artículo seis de este acuerdo de condiciones de trabajo habla de una utilización

no exclusiva preferente de los medios propios en los servicios que precise la administración pública para el desarrollo de su actividad por tanto esto es lo que está haciendo la administración

seguir utilizando preferentemente no exclusivamente los medios propios para desarrollar las actividades vinculadas a sus servicios eso sí inmediatamente después hay un compromiso de no externalizar que afecta a

que se pueda plantear o actividades existentes que no estén subcontratadas pero incluso esta previsión ha de ser interpretada a la luz de lo que establece el apartado tercero de este mismo artículo seis

al gobierno la elaboración de una norma expresa sobre la contratación de servicios

necesaria si la prohibición fuera tan taxativa como usted establece o como usted afirma de cara a la externalización porque la externalización no sería necesario regularla como

si estuviera prohibida prueba de que no está prohibida es que el propio acuerdo de condiciones de trabajo que dice que la utilización de medios propios es preferente no exclusiva encomienda al propio gobierno la elaboración de una normativa para regular la estandarización

es el acuerdo de consejo de gobierno que fija estas instrucciones de buenas prácticas para la contratación de servicios y ese es el marco en el que opera el gobierno vasco de instrucciones y buenas prácticas dice que excepcionalmente se admitirán contrataciones de servicios que tengan por objeto actividades no implantadas y que implantadas no estuvieran contratadas a dicha fecha por tanto se admiten excepcionalmente

y esta es la regulación que ha hecho el gobierno en el marco del acuerdo de condiciones de trabajo y este es el marco en el que va a seguir actuando el gobierno gestionando de la manera más equitativa de la manera más equilibrada razonable y eficiente posible

que definen el entorno normativo en el que tiene que moverse el sector público autonómico de cara a la cuestión que usted plantea a la externalización o no de los servicios públicos que pueden producirse y de hecho se producen controversias a la hora de interpretar algunas de sus previsiones

qué debemos entender por actividad existente y no subcontratada

previstos en los propios convenios o en su caso en los tribunales de justicia en algún caso las discrepancias no han sido resueltas internamente y han sido judicializadas

los tribunales de justicia en aquellas cuestiones que están judicializadas pero en todas las demás cuestiones sigamos procurando alcanzar acuerdos y visiones compartidas en torno a la aplicación de las previsiones normativas que acabo de citar que son insoslayables creo que usted tampoco pondrá en cuestión que el marco en el que tenemos que movernos independientemente del planteamiento ideológico de cada uno

ahí nos vamos a mover y con ese propósito con esa intención de gestionarlo gestionar ese marco de la manera más equitativa razonable y eficiente posible

aclarar dos cuestiones que usted ha dicho que yo he dicho

no he dicho que estemos de acuerdo con usted en que no ha habido externalizaciones desde el año

en esta cámara hemos debatido en comisiones y seguramente volveremos a debatir y ustedes tendrán que seguir debatiéndolo con los sindicatos si tienen a bien reunirse con ellos

y en segundo lugar yo no he hablado de un modelo que prohíba ningún tipo de externalización ningún tipo de contratación externa no he hablado de prohibición conozco bien lo que significa la palabra preferente preferentemente o creo que lo conozco bien

mi interpelación como le he dicho era sobre la intencionalidad del gobierno a futuro con este tipo de cuestiones y usted creo que se ha remitido sobre todo al marco normativo

no sé si coincidirá usted conmigo que se pueden hacer políticas diferentes con un mismo marco normativo más allá de que yo sería partidario de cambiar el marco normativo desde luego pero creo que con el mismo marco normativo se pueden hacer políticas diferentes sino pues no sé si tendrían

de este sistema el sistema de partidos si simplemente hay un marco legislativo y ese marco no permite operar políticas diferentes pues en mi opinión desde luego mal sistema democrático

y por lo tanto nuestra interpelación es sobre la intencionalidad del gobierno en cuanto al sistema público y yo por eso he hecho una especie de

efectivamente pero sí que nosotros entendemos que en la administración pública orientada

lógicamente hay una política concreta y es una política de un modelo público privado es decir una parte importante de la administración pública realiza tareas a través de empresas privadas tareas que en nuestra opinión en muchísimos de esos casos son tareas que podría hacer la administración pública directamente y de manera especial para ello la administración pública tendría que poner las medidas oportunas para así realizarlas y por eso yo he hecho referencia a aquel acuerdo de dos mil diez porque en el espíritu de ese

queda muy bien reflejado en el articulado y más allá de que eso sea

una parte de la administración lo que allí se dice en nuestra opinión es un definición que podría valer perfectamente para el tipo de políticas que a nosotros

dotar desde elementos propios las necesidades de la administración pública preferentemente efectivamente preferentemente quiere decir que todo lo que se pueda dotar con elementos propios tendremos que intentar hacerlo con elementos propios verdad en los criterios que usted me ha planteado solo al final de su intervención en la única parte que no se ha referido a marco normativo

que en mi opinión son subjetivos y lo que para usted puede ser eficacia o lo que para usted puede ser

no lo sea y a esto me refiero y por eso nos interesa saber la opinión del gobierno y qué políticas va a hacer a este respecto porque en nuestra opinión la externalizacion de los servicios en la mayoría de los casos es negativa es negativa simplemente por el hecho de que un administrador privado tiene que obtener unos beneficios y de algún sitio salen esos beneficios y esos beneficios

son peores que si fueran trabajadores de la administración pública y de ahí se saca la diferencia o el servicio es peor y de ahí se saca la diferencia o si no

esos beneficios que la administración pública directamente no tiene esa necesidad imperiosa de obtener

hemos aquilatado después de esta segunda intervención ya las posiciones de cada uno efectivamente yo he hecho una referencia al marco normativo creo que era obligada

usted ha afirmado que no es partidario que no le gusta a mí me guste o no es el que tenemos como referencia y por tanto me parece que situarme

general dictada por las cortes generales se añade un acuerdo de condiciones de trabajo

pero a partir de ahí empiezan las discrepancias usted me dice yo no he defendido la tesis que usted me atribuye yo reconozco lo de preferentemente si quiere repasamos su intervención inicial y vemos si ha hecho referencia o no al preferentemente seguro que no seguro que no porque lo he repasado

del año dos mil diez se circunscribe estrictamente al personal

del sector público autonómico vasco y el que sí que se refiere al conjunto es el acuerdo del año dos mil nueve

el marco que completa las previsiones de la ley a este respecto y del que arranca el acuerdo adoptado en el seno del consejo de gobierno fijando las instrucciones para las buenas prácticas en el ámbito de la contratación de servicios públicos a partir de ahí usted me dice yo creo que el preferentemente significa

solamente donde no es posible llevar a cabo una actividad con recursos propios es lícita la externalización bueno yo creo que en absoluto esa interpretación es la pertinente porque

en todo es posible prestar una actividad con los recursos propios en todo

pero también la administración puede engordar su plantilla con personal propio para hacerlo con recursos propios fíjese en el pasado existían los camineros en las diputaciones forales que se ocupaban de la

vinculada con las infraestructuras de comunicación posible todo es posible y ha habido modelos puntuales en la historia en las que todo estaba internalizado ha habido y todavía seguramente en el derecho comparado habrá algún país en el que todavía esto es así nada

y todo lo hace la administración con recursos propios por tanto todo es posible entonces como una interpretación de ese tipo

preferentemente dice de manera expresa que la administración regulará las condiciones de la externalizarían y por tanto la externalización es posible

de esa previsión del acuerdo de condiciones de trabajo no cabe y por eso se dictó el acuerdo de instrucciones de condiciones de trabajo que vino inmediatamente después y dice que regula las condiciones para

el gobierno insisto mientras no se modifique este marco va a seguir operando con él usted me dice bueno y por qué no se convocan los foros bilaterales de cooperación que existen que están previstas

entre los supuestos que usted ha citado muy heterogéneos entre sí de utilización sistemática de la externalización o de la privatización hacía referencia al eustat

en el instituto de estadística fíjese se refiere exclusivamente a que en un año determinado una encuesta que el eustat venía desarrollando con medios propios

inmediatamente después se llevó a la comisión de seguimiento bilateral prevista en el acuerdo de condiciones de trabajo para revisar las cuestiones relativas a la externalización y fue el único año en el que se llevó a cabo los sindicatos presentaron su queja la administración la acogió y a partir de ahí no se ha vuelto ninguna externalización es un episodio puntual

muy especiales que concurrieron ese año por tanto usted ha citado casos muy excepcionales y muy diferentes entre sí

y que permiten afirmar como he hecho yo al principio que el gobierno en absoluto está inmerso en una política sistemática de externalización

el pasado veintiocho de noviembre la empresa alfa precision casting

trabajadores y trabajadoras de su plantilla y apenas diez días después ha anunciado la liquidación judicial de la empresa qué papel ha jugado el gobierno vasco

como va a terminar eskerrik asko

y evidentemente en el proceder de la administración y usted sin duda o se supone que lo debe conocer puesto que es trabajador de la misma

no ha intervenido de ninguna forma en la adopción de esta decisión en el que haya presentado su liquidación es más tengo que reiterar como en otras tantas ocasiones que

estas decisiones competen a la empresa siendo la empresa trabajadores equipo directivo y propiedad por tanto en ningún caso hemos intervenido
ni nos corresponde intervenir en las decisiones que se adoptan en una empresa eskerrik asko

donde le preguntamos por las empresas en crisis usted dijo que

donde ustedes atendían las necesidades de las empresas cuando tenían dificultades y hacían un seguimiento continuo de muchas de ellas esta es una de las empresas que ha recibido ayudas públicas

forma parte de un grupo que tiene esas ayudas públicas y que las ha recibido en el pasado y además usted en su momento dijo que

de dos mil doce se produjo una restructuración que dio lugar a que esta empresa saliera a través de un convenio de acreedores en ese convenio de acreedores

que formaban parte del que hizo que el gobierno formarse parte de la propiedad de la empresa

se perdiera un cuarenta por ciento en ese convenio de acreedores de manera que los ocho millónes de dinero público pasaron a ser cuatro coma dos millónes en diversos créditos por lo tanto es una empresa privada pero no tanto ha sido una empresa que ha tenido una parte de la propiedad por parte del gobierno vasco hasta el dos mil catorce y a

con los fondos del gobierno por valor de cuatro coma dos millónes de euros por lo tanto

tengo que decirle además que en esa labor de seguimiento que ustedes han anunciado en más de una ocasión

por ejemplo del principal problema que alega la empresa que es la búsqueda de clientes dicen que han perdido clientes y me preocupa una cosa y es que dicen que por solo cinco días de huelga

en la restructuración de dos mil trece los trabajadores pasaron a cobrar entre un diez y treinta por ciento menos de sueldo y sin embargo en dos mil quince

se repartieron dos coma tres millónes de euros en concepto de primas de éxito con ese dinero

hasta dos mil veinte que necesitaba la empresa para seguir siendo viable y tenemos aquí como en muchos otros procesos de cierre que la plantilla hace sacrificios

que la plantilla que ha hecho los sacrificios pierde el empleo mientras que la dirección sigue en su puesto y qué papel juega usted o su departamento en todo esto

esos cuatro coma dos millónes de euros van a tener una intervención activa o va a seguir siendo tan pasiva como en otros cierres van a seguir acompañando hasta el precipicio hasta que la empresa

implicará la desaparición de todo el grupo porque es la principal empresa y la realidad es que si ustedes

sí porque son posiblemente el acreedor mayoritario se podría hacer una auditoría de todas las irregularidades que se han cometido en esta empresa

además confundir a cualquiera empezando por el final el administrador concursal

ni lo proponemos por favor vamos a ser un poco rigurosos vamos a ser un poco rigurosos en segundo lugar me preguntaba

ninguna ninguna porque no la puede tener otra cosa es otra cosa es que usted ha pretendido mezclar

tanto con el equipo directivo como hablando con los trabajadores son dos cosas realmente diferentes y no pretenda mezclarlas

con un convenio de acreedores como también ha citado los cinco días de huelga se convirtieron en quince en esa localidad puesto que coincidieron con un puente

cinco días que depararon en quince días de parón eso significó que en un determinado momento

y por tanto y por tanto solicitará la liquidación porque viene ya de un concurso y se encuentra en un convenio de acreedores pero todavía el juez no ha aceptado esa liquidación ni ha aceptado esa liquidación

en segundo lugar en este momento qué nos toca la dirección y puedo estar de acuerdo con usted

en que el reparto de dividendos en un momento tan crítico para la empresa quizá no fue a decisión más acertada quizás se podría haber hecho de otra forma en eso estoy de acuerdo con usted nos encontramos en un momento en el que ya va a estar en manos del juez y del administrador concursal trabajar qué nos toca hacer como administración como acreedores que somos de una parte como también lo es la banca y como también

en la reunión que se ha mantenido en esta semana en la búsqueda de la mejor solución posible en estar trabajando para que esta empresa pueda tener una viabilidad

y usted sabe tan bien como yo que esta empresa tiene dos áreas de acción una de ellas en números no rojos vamos a decir con una viabilidad probada y otra área que la viabilidad no se encuentra tan probada en pérdidas desde el inicio de la salida

y porque se salven el mayor número de empresas como siempre lo hemos hecho y eso es lo que nos corresponde hacer pero en este momento quiero insistir la empresa ha solicitado al juez la liquidación el juez aún no se ha pronunciado y aún no ha nombrado administrador concursal si el administrador concursal nos permite trabajar porque nos tiene que dar autorización nos lo solicita la empresa y nos lo solicitan los trabajadores que lo han hecho

andar bastante por eibar a cuenta de esta cuestión

muy habitual para darme su opinión sobre la situación política pero sí he visto otras cosas también que me han llegado viniendo de otra zona también con una amplia tradición

justo enfrente de las instalaciones de alfa hay un gran mural erakusten dituena historian zehar hor bertan egindako

mala porque se han vendido empresas rentables del grupo porque se ha repartido como se ha dicho antes cuando había problemas de tesorería un bonus de más de dos millónes entre los directivos directivos que

euros por persona y año porque esta dirección ha roto la comunicación y las relaciones con los trabajadores porque no han sido honestos y sinceros con los trabajadores y trabajadoras porque han renunciado en invertir y apostar por el futuro de la compañía

consejera esta va a ser una interpelación que quiere fundamentalmente ser informativa en relación con el proceso que se está siguiendo con algo que ya

hablado hemos valorado en este parlamento el conservatorio de danza josé uruñuela es conocido por su dedicación a la enseñanza a la difusión de la danza labores a las que se dedica

una formación profesional de calidad además asegura a las y los jóvenes una titulación y reconocimiento oficial de sus estudios fomenta el interés por la danza en euskadi favorece la colocación cultural de vitoria a nivel

entre otras cosas y permite que la ciudadanía disfrute con ese trabajo

los beneficios me refiero a lo que también vemos en las cuestiones que tienen que ver con la página web del propio conservatorio de danza que aporta el conservatorio profesional de danza al país vasco son muchos

nuestros jóvenes aseguran una titulación y un reconocimiento oficial de sus estudios compatibilidad con los estudios de danza y la educación en general el interés por la danza en el país vasco la formación de futuros profesionales de la danza se habla incluso de la futura creación de una compañía estable

objetivos loables importantes de tener una base asentada los profesionales de la danza no tendrán

su profesión disfrutaremos con su trabajo y sus éxitos seguramente con el tiempo algunos de ellos de esos profesionales serán buenos maestros

los estudios de enseñanzas profesionales de danza con la eso en horario concertado de mañana y con el bachillerato en horario nocturno y bueno los números están ahí

cursos la duración de los estudios de danza es de cuatro años para enseñanzas elementales seis cursos para enseñanzas profesionales

precisamente esa formación de calidad para el futuro profesional

nosotros hemos presentado esta interpelación recordando además en la interpelación como hace ahora tres años fue la comisión de educación aprobó la proposición no de ley sobre el futuro del conservatorio municipal de danza

dijo el parlamento vasco insta al gobierno vasco a reconocer el patrimonio y la trayectoria profesional de veintisiete años del conservatorio municipal josé uruñuela de vitoria gasteiz consolidar el proyecto de futuro garantizando su futuro parece

hasta aquí el gobierno vasco ha tenido determinados compromisos

bueno vamos a ver eso de consolidar el proyecto y garantizar su futuro vamos a verlo el segundo

política lingüística y cultura acordar con el ayuntamiento de vitoria gasteiz en un plazo

dependiente del departamento de educación política lingüística y cultura de la comunidad autónoma es ese momento asumiendo así su titularidad

sobre lo que nosotros queremos información sí que es cierto que el pasado mes de julio el gobierno respondió a una pregunta parlamentaria escuetamente

administraciones continúan trabajando decía

están trabajando para establecer un compromiso entre ambas instituciones para impulsar resueltamente el proceso de integración

docentes públicos dependientes del departamento de educación así como para impulsar la adecuación del proyecto educativo del centro asegurando al alumnado del país vasco una trayectoria educativa desde las enseñanzas elementales hasta las enseñanzas artísticas

vale eso es lo que ya sabíamos que tenía que hacer el gobierno eso ya lo sabíamos

con dicho objeto y con el fin de dar cumplimiento al mandato parlamentario bien otro concepto jurídico indeterminado pero bueno ambas administraciones

sobre los diferentes aspectos que conforman la impartición de las danzas del conservatorio profesional de danza josé uruñuela bueno eso era en julio esa respuesta

hayamos avanzado en estos meses además en un momento como es el de ahora que la comunidad educativa

en futuras preparaciones de nuevos cursos y de futuros cursos ya sé que habrá dificultades para que el

cuáles son los propósitos del gobierno vasco en relación con la definitiva integración en la red pública de educación reclamada hace tres años por el parlamento vasco de las enseñanzas

supongo que no será fácil todas estas negociaciones habrá que concretar muchas cuestiones pero es más

va a ser bueno para los profesores va a ser bueno también para el sistema educativo

de las diferentes instituciones y en ese sentido sí que nos gustaría que vuelvo a decir en esta interpelación que quiere buscar la información por parte del gobierno vasco pudiese concretar algunos elementos más de algo que forma parte de un futuro que esperemos inminente en relación con

esparrua la organización de las enseñanzas elementales son de total competencia de la comunidad autónoma del país vasco y actualmente están reguladas por el decreto

por el que se establece el currículo de las enseñanzas elementales de danza y el acceso a dichas enseñanzas

en la que no me quiero extender pero sí a modo de ejemplo citar el real decreto ochenta y cinco barra dos mil siete de veintiséis de enero por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas profesionales de danza reguladas por la ley orgánica dos barra dos mil seis del tres de mayo de educación

o el decreto veintitrés barra dos mil dieciséis de dieciséis de febrero

y se establece el plan de estudios para la comunidad autónoma del país vasco dado que solo existía y existe un centro público que imparte estas enseñanzas el currículo se elaboró teniendo en cuenta la oferta del centro josé uruñuela por lo que la oferta formativa se centró en la especialidad de danza clásica

klasikoak edo garaikideak ia garrantzi kualitatibo eta kuantitatibo bera dute con una visión integradora y de acuerdo a la normativa de referencia para mantener la coherencia y complementariedad con el plan de estudios para la danza ya establecido el primer análisis del departamento se ha centrado

la redundancia diseñar y proponer la revisión del plan de estudios del centro fruto de este diagnóstico el planteamiento educativo del centro josé uruñuela debiera

sin que para ello sea necesario sustituir la especialidad actual que es danza clásica

en este sentido se proponen cinco objetivos para el proyecto educativo de josé uruñuela como consecuencia del análisis realizado

el primero de ellos fortalecimiento de la danza contemporánea dentro de la especialidad de la danza clásica

en coherencia y complementariedad con la oferta formativa de dantzerti sería deseable

tal y como ocurre en otras comunidades autónomas el segundo objetivo la creación de asignaturas optativas

enriquecería la oferta formativa y evitaría la rigidez actual estas asignaturas optativas servirían para reforzar determinadas líneas de trabajo

lo que permitiría trasladar a dicho ámbito de las materias optativa

de algunas materias que se imparten actualmente y que podrían ser prescindibles dentro de las opciones de asignaturas optativas identificadas se encuentran interpretación

hasta hoy inexistente taller de coreografía uno y dos

y las danzas de raíz tradicional el tercer objetivo es la búsqueda de una mayor coherencia interna mediante la organización de ciclos de dos cursos con la distribución horaria adecuada

asegurando una formación sólida pero suficiente y susceptible de ser asumida por un alumnado que la compatibiliza con las enseñanzas de régimen general

huyendo de horarios agotadores y jornadas obligatorias de mañana y tarde al tiempo que se incentiva la finalización de estas enseñanzas y por último el planteamiento lingüístico que avance desde el monolingüismo castellano actual de las enseñanzas hacia el bilingüismo de una manera progresiva

esta situación no se corresponde con la demanda progresiva de euskaldunización del sistema educativo por lo tanto se deberá plantear una progresiva ampliación de la oferta mediante el desdoble de danza clásica desde el primer curso y de la danza contemporánea desde tercero además de las materias optativas de quinto y sexto la danza tradicional de tercero y quinto se impartiría exclusivamente en euskera

permítame que me haya extendido en la explicación y en la propuesta del plan de estudios de enseñanzas profesionales de danza en la comunidad autónoma del país vasco

porque es un elemento básico que determina tanto las necesidades del profesorado con relación a las enseñanzas básicas y profesionales

que imparten o pudieran impartir dicho plan de estudios y los medios materiales asociados que debieran ser planificados para su desarrollo desde que el departamento recibió el encargo de este parlamento que usted cita en su justificación se han llevado a cabo reuniones con los responsables del conservatorio municipal de danza josé uruñuela

gracias presidenta muchas gracias señora consejera muy bien la primera parte de la respuesta primera parte es que se está trabajando

se ha hecho trabajo se reconoce que no hay

ha habido reuniones de trabajo se ha visto que ha habido un análisis y una revisión del plan de estudios se ve necesario

modificaciones fomentar la carga horaria y además además identificamos

cinco objetivos que van en consonancia con lo que va a ser luego la

con las características especiales que usted ha comentado la creación de estas asignaturas optativas y sin duda alguna formando parte de la normalidad

de estudios más coherencia interna efectivamente ajuste horario planteamientos lingüísticos ambas cuestiones que tienen que ver como usted también ha hablado con el profesorado etcétera etcétera no cabe ninguna duda

en el contacto de esas reuniones con la dirección del conservatorio es un paso importante

ya sabemos porque lo vemos que la integración va a ser buena para todos la integración va a ser buena en relación con lo que se fundamenta en este análisis previo y

esa integración va a favorecer al alumnado y a sus familias ya se habla también de que en este momento las tasas son muy altas de que es posible que pueda haber en su momento una reducción

técnicas el profesorado también busca un mejor reconocimiento profesional laboral y esa integración parece ser que es un elemento óptimo pues para que eso

y las instituciones lógicamente funcionarán en orden a sus competencias el gobierno competente el gobierno vasco en materia de educación ordenando y fomentando y además siendo quien asuma esa competencia y ese centro y el ayuntamiento no competente pues pudiendo colaborar con el departamento de educación en las cosas que puedan ser no regladas

que dirigir una cuestión reglada que no son sus competencias estrictamente así que el asunto

nos tiene que responder a la segunda parte de la interpelación señora consejera que supongo que algo nos dirá

independientemente que ha tenido valor lo que nos ha dicho en la primera parte calendario

cronograma con qué tiempos juegan usted lo habrá hablado con el alcalde de vitoria o con la dirección

colaboradores del departamento es decir cuándo se va a poner en marcha ya la definitiva integración en marcha podemos entender que está o sea que ha habido esos análisis esos trabajos así que cuándo y el gobierno vasco cuándo nos puede anunciar usted que se va a proceder a esa integración que ya
se exigió hace tres años muchas gracias eskerrik asko barrio jauna uriarte anderea zurea

señor barrio tal y como le he trasladado en mi primera intervención el proceso de integración no es un proceso sencillo

a fin de definir el mejor itinerario posible para su integración en la red pública dependiente del departamento tenemos que ver esta complejidad como una oportunidad al no tener un modelo concreto en el que poder reproducirlo

por ello se deben dar los pasos adecuados para una efectiva materialización de la integración

de definición del plan de estudios del centro es la relativa a la planificación de los recursos humanos y a la adecuación de las titulaciones del profesorado la normativa que regula las

y profesionales de danza es amplia y por citar alguna de ellas

de catorce de junio por el que se establece las especialidades docentes del cuerpo de profesores de música y artes escénicas vinculadas a la enseñanza de música y danza el real decreto

de nueve de julio por el que determinados documentos oficiales se declaran equivalentes a las titulaciones a las que se refiere en el artículo noventa y seis punto uno de la ley orgánica dos barra dos mil seis para impartir las enseñanzas elementales y profesionales de danza establecidas en dicha ley

del dos mil diez por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que imparten enseñanzas artísticas reguladas en la ley orgánica de dos barra dos mil seis de educación o el decreto cuatrocientos cuatro de dos mil trece del treinta de agosto ya citado anteriormente por el que se establece

el análisis de la titulación del profesorado que también se ha realizado actual determina que cumple los requisitos establecidos por la normativa básica en las líneas generales

vienen ocasionadas básicamente por la configuración del barrio de bidebieta una zona de edad media alta en un entorno pluriurbano

con las posibilidades de elección de centro que de ello conlleva y el hecho de que la bajada de la natalidad nos está llevando a un exceso ya de oferta de plazas escolares en todos los entornos hay plazas en las escuelas y muchas escuelas alrededor lo que ocasiona que las familias tengan un amplio

de la confluencia del alumnado de karmengo ama para cursar la educación secundaria obligatoria además del centro con el que comparte itinerario actualmente mendiola que tiene una media de acceso en torno a diez alumnos máximo tras varias actuaciones a lo largo de diferentes cursos en el ies bidebieta y con la evidencia en cada periodo de matrícula de que el paso del alumnado al centro era cada vez menor

se intentó reforzar y apoyar un proyecto para que el centro no se viera avocado a una situación en la que el alumnado procediera básicamente de la escolarización fuera de plazo

se han venido realizando diversos esfuerzos para mejorar la imagen y mantener la oferta estos últimos cursos con la finalidad de que el centro sea atractivo para las familias del barrio de bidebieta

a las familias del entorno se ha realizado la mejora de las instalaciones deportivas y propuesto e iniciado la unificación de toda la oferta de la eso y bachiller en un mismo edificio cohesionando toda la oferta por otro lado analizando el itinerario educativo en el que se encuentra el ies bidebieta tenemos el ceip mendiola de haur eta lehen hezkuntza este centro está situado en el barrio de bidebieta entre los dos edificios

son dos hexagonales en el primero está educación infantil y la mayoría de educación primaria

en este curso son noventa y cuatro el total de alumnos y alumnas en el centro y todos los grupos del modelo quinientos no llega a una media de diez alumnos por nivel que sería el alumnado potencial para el ies bidebieta por otro lado

el edificio principal de serapio mugika que contiene las instalaciones de bachillerato actualmente cuatro grupos

y en el edifico amarillo de julio de urquijo está la etapa obligatoria de la educación secundaria actualmente se escolariza el alumnado de toda la etapa

desde este principio de curso la delegación territorial ha tenido una interlocución abierta y ha venido realizando una serie de reuniones con la dirección del centro para analizar todas las cuestiones referidas a las posibilidades de continuidad del centro su situación concreta a día de hoy y sus previsiones para los próximos cursos

la delegación realizó una análisis técnico en el que se detectaban dificultades para que la demanda de la matrícula en el centro para el curso dieciocho diecinueve fuera superar la decena de alumnos y alumnas cuando los mínimos para la eso son de diecisiete alumnos para abrir grupo

en el sentido de que en ninguno de los colectivos implicados saliera perjudicado de estos parámetros de falta de alumnos para constituir grupo de cara al curso dieciocho diecinueve y viendo el momento como una oportunidad para reubicar a satisfacción de docentes y alumnado la delegación propuso presentar esta plan al claustro de profesores y al órgano máximo de representación del centro

del dos mil diecisiete en el propio centro aunque técnicamente estos resultados podrían dirigirnos a impulsar o proponer ese cierre paulatino del centro este gobierno

tenemos claro nuestro compromiso por el impulso a la escuela pública vasca las frías cifras nos pueden marcar una dirección pero aquí además de los números debemos tener en cuenta muchos otros factores

eta familientzat erakargarria izango dena insisto estimamos que hay que analizar todas las posibilidades

a pesar de las dificultades objetivas que entraña debido a los factores mencionados anteriormente pero si queremos darle una oportunidad y crear un proyecto ilusionante es necesaria e imprescindible la implicación del centro y de de toda la comunidad educativa

es por ello que hemos promovido una serie de reuniones y contactos con los agentes implicados para entre todos analizar la situación actual y la posibilidad de impulsar

hitz egiteko por parte de la dirección del centro se presentó la trayectoria del mismo

entre otros la implantación de la etapa de secundaria obligatoria en karmengo ama de pasaia de donde provenía parte de su alumnado y las consecuencias que había supuesto para el ies bidebieta hau da lehen esplikatu dudana

le reitero que es imprescindible que se elabore con la comunidad educativa un proyecto estratégico

para que el alumnado de otras zonas acuda al centro gaur egun hezkuntza laguntzarako hainbat proiektu instituzional garatu eta ari dira garatzen bereziki ikasteko

hau da aukerak badaude la apuesta de la administración por impulsar el nuevo proyecto educativo del ies bidebieta es clara

ilusionante y exitoso y a su vez viable es necesaria la implicación de toda la comunidad educativa compartimos la necesidad de definir un proyecto educativo para el ies bidebieta que sea atractivo para las familias del barrio

para terminar quiero dejar constancia que desde el departamento vamos a apoyar y poner a disposición todos los medios necesarios para que los centros públicos puedan contar con proyectos adecuados que permitan garantizar la oferta educativa haciendo especial esfuerzo en aquellos que se hallan en situaciones más adversas nuestra escuela pública lo merece

si bien para ello será necesario obviamente además de contar con el alumnado necesario que la propia comunidad educativa decida

para preparar el reconocimiento mutuo de la enseñanza superior y de los diplomas de fin de estudios la realización y habiendo como hemos procedido acabar el proceso de bolonia la adaptación también de los créditos

la reflexión de la comisión europea es que todavía no ha culminado este sistema a pesar también de haberse puesto en marcha en dos mil ocho el marco europeo de cualificaciones se establece que ya hay un reconocimiento mutuo de grados másteres y doctorados pero que sigue habiendo problemas para diferentes estudiantes fundamentalmente de secundaria y nos gustaría saber también el análisis del gobierno si está siendo un problema si está siendo un problema

problema para las universidades del sistema universitario vasco si hay posibilidades de interlocución directa o cómo incluso si puede ser un problema la estructura actual de cuatro más dos en el proceso o no

al aprendizaje de idiomas se plantea una mejora fijando como nueva referencia para dos mil veinticinco que todos los jóvenes europeos que terminen el segundo ciclo de enseñanza secundaria deben tener un dominio de dos lenguas además de sus lenguas maternas también para ello se establece que hay que apoyar los profesores multiplicando el número de profesores

que la que es la plataforma online para profesores y que sobre todo el caso de los profesores

idiomas les permite comunicarse colaborar y desarrollar proyectos no sabemos si tienen datos de participación actual de profesores en la red

ayer precisamente salió hubo un debate sobre este tema y en mayo de dos mil dieciocho

aprendizaje de idiomas en europa que se tendrá en cuenta además desde los niveles de infantil hasta cómo conseguir el objetivo final de los dos idiomas en educación secundaria una reflexión

en la comparativa entre diferentes países también las reflexiones que si bien el tiempo dedicado parece ser el adecuado no así los niveles de competencia adquirido a nivel global y se plantea fundamentalmente un aumentar la eficiencia en la impartición de idiomas incorporando

y también herramientas digitales hemos visto también que plantean como posibilidad el desarrollo de proyecto piloto de enseñanza bilingüe en zonas transfronterizas

la posibilidad de participar en el mismo o junto a ipar euskal herria

también se plantea la creación de centros universitarios europeos con el fin de que las universidades europeas de categoría mundial puedan trabajar conjuntamente sin fisuras a través de las fronteras se han desarrollado acciones de cooperación transfronteriza tenemos aquí en marcha también másteres de eramus mundus y hay un trabajo hecho

por último está el punto de invertir en educación se plantea también en esta reflexión de la comisión como referencia a que los estados miembros deben invertir un cinco por ciento de su pib en educación esta es la media actual el cinco por ciento de inversión

o a pesar de que nos digan que el cinco por ciento y a pesar también de que la comunidad de euskadi sea la comunidad que más invierte

si hay alguna reflexión respecto a esto eskerrik asko eskerrik asko

hazkunde ekonomiko eta jakina gizarte justizia jyrki katainen vicepresidente de la comisión europea y comisario responsable del fomento de empleo crecimiento inversión y competitividad

comisario de educación cultura juventud y deporte han declarado recientemente la necesidad de hacer un esfuerzo colectivo para avanzar en el futuro desarrollo de europa

también en el ámbito de educación en su opinión para dos mil veinticinco viviremos en una europa cuyas fronteras no serán obstáculos para aprender estudiar o investigar sino que la norma será ir a otro estado miembro para estudiar aprender o trabajar

como he dicho antes las competencias de la comisión europea son limitadas a la hora de establecer políticas educativas y su alcance se limita a apoyar la cooperación y a complementar políticas educativas impulsadas

u horizon dos mil veinte pues bien las conclusiones de la reunión de gotemburgo sobre educación y cultura han arrojado seis sugerencias ligadas a lo que la comisión entiende que son políticas clave para europa y que ahora deben ser objeto de reflexión y orientación estratégica por parte de las administraciones competentes y así las tomamos

pues bien tengo que decirle que este gobierno comparte la visión de la comisión de europa en lo que se refiere a otorgar prioridad a las políticas sociales

y también tengo que decirle que nuestra legislación en materia educativa en lo que se refiere a la educación superior incide de manera notoria en esa visión europeísta la ley

que persigue la inserción del sistema universitario vasco en el sistema europeo de la enseñanza superior como marco de referencia y espacio de movilidad de trabajadores y profesionales en esa ley vasca del dos mil cuatro se abordan los puntos clave de la reflexión estratégica que usted avanza tanto la movilidad de las personas es decir programa actualmente conocido

la equiparación u homologación de títulos de la enseñanza superior en todo el ámbito del espacio económico europeo la financiación del sistema universitario vasco

en definitiva esta ley pone las bases para trabajar por el desarrollo del sistema universitario vasco de sus universidades

para terminar esta primera intervención quiero decirle que la visión del gobierno vasco es que debemos defender las competencias

es decir en un marco de colaboración con el contexto europeo y este es sin duda el punto de partida y seguirá siendo nuestra guía de nuestras políticas de acciones de futuro

el marco del espacio europeo de educación superior nos avala la homologación y el reconocimiento amplio de titulaciones universitarias si bien en esta materia nuestras competencias son reducidas

pero sin embargo debo decir que estamos trabajando junto con unibasq en el desarrollo de la formación dual universitaria elaborando y presentando el pasado veintiocho de noviembre la mención dual en formación universitaria

lo que nos está posicionando de nuevo en el contexto europeo en un ámbito novedoso y muy atractivo para la sociedad

que alcanza a la parte estructural a la parte basada en objetivos y a la parte competitiva el fortalecimiento del sistema universitario

a través de la financiación dirigida tanto a las universidades que conforman el sistema

de ciencia ikerbasque los programas competitivos asociados a la promoción de la investigación en excelencia o el campus de excelencia euskampus todos ellos programas con una clara vocación europeística

zure galderan helmuga izan diren sei ardatz estrategikoekin el cumplimiento de las acciones acordadas a través de la financiación recogida en los presupuestos de dos mil dieciocho será clave de cara a la evaluación final de este plan universitario en lo que se refiere a trabajar por las universidades quiero destacar el compromiso de impulsar los programas universidad empresa

y que apoya el desarrollo de dicha estrategia en este sentido se fomentará la puesta en marcha de titulaciones duales e iduales

y quiero subrayar las titulaciones iduales y de internacional es decir vamos a apostar por la internacionalización de estas titulaciones también en el contexto europeo finalmente destacar una nueva partida destinada a poner en marcha programas de investigación de excelencia colaborativa en áreas prioritarias y territorios de oportunidad del ris tres

con una inversión prevista por valor de dos coma ochenta y cinco millónes de euros por otro lado la apuesta del departamento de educación por la investigación de excelencia y transferencia tiene una incidencia clara en nuestra posición en el contexto europeo y quiero destacar que se ha incrementado el presupuesto de investigación por encima del compromiso de este gobierno del cinco por ciento anual

más que en el periodo dos mil diecisiete la estrategia del departamento que dirijo en materia de política científica ha permitido que el peso de euskadi a nivel estatal y mundial haya crecido de manera sostenida a lo largo de la última década gracias a unas tasas de crecimiento superiores superando las cinco mil doscientos publicaciones indexadas vuelvo a decirle como he hecho en mi primera intervención

y debemos defender nuestras competencias en materia de educación y desarrollarlas plenamente en un marco de colaboración en el contexto europeo

señora consejera el pasado diez de noviembre el tribunal superior de justicia del país vasco confirmó la sentencia por la cual anulaba

que permitía la ampliación de la ikastola urretxindorra y la construcción de un centro comercial en sus terrenos frente a este trato de favor proporcionado por el ayuntamiento a un centro

tenemos los retrasos injustificados que su departamento aplica desde hace diez años a todos los centros públicos del distrito ibaiondo cómo puede justificar usted estos retrasos y ese doble rasero que aplica su partido en las diferentes instituciones entre la educación pública y la privada gracias

respecto a las necesidades de escolarización el programa prevé sesenta y dos actuaciones de ampliación adecuación y creación de nuevos centros educativos para hacer frente a la demanda de nuevas plazas escolares de apartado de obras de reforma mejora y adecuación la normativa que además de la renovación

en los trabajos que permitan una correcta accesibilidad a los centros de enseñanza se planificaron setenta y ocho actuaciones a estas actuaciones han de sumarse además las denominadas obras menores

señora consejera no puedo coincidir con usted en que ibaiondo no esté abandonado porque

diez años después ninguno de los tres centros proyectados está en marcha el primero si llega será pagasarribide diez años después de que empezaran a surgir los problemas de masificación y saturación el barrio de miribilla

y frente a los diez años de retrasos que le menciono el centro privado urretxindorra en menos de dos años consiguió una recalificación y construyó un edificio nuevo para dar servicio

los centros educativos públicos yo entiendo que las obras que se realizan en centros privados como urretxindorra no son de su responsabilidad pero sí lo son las de los centros públicos

es que a día de hoy seguimos en el distrito ibaiondo

tengo conocimiento de primera mano de ello porque yo fui uno de los padres que en dos mil nueve

a suplicar porque no se puede denominar de otra manera que empezaran a abordar el problema que se veía venir y

ya tenemos encima desde hace diez años pero el caso de urretxindorra no es un caso aislado también se planificó un centro de formación profesional un solar en el lugar más contaminado de todo miribilla luego ha resultado que como eran seis millónes de euros para descontaminar ni el ayuntamiento ni el gobierno lo ha afrontado sí afrontó ese hueco

el espacio que se le dejaba para implantarse y quedarse con toda la formación profesional del barrio y claro el problema es que

y como digo lo que está sucediendo en el centro en el distrito de ibaiondo no es un caso aislado es un plan sistemático que tiene su partido

educativa a través de la saturación la masificación y la creación de guetos para que las familias huyan de la educación pública hacia la red concertada privada

la gallardía de reconocerlo como lo reconoce el partido popular que prefiere la red concertada no pasa nada por reconocerlo lo que no puede ser es que ustedes jueguen al engaño una y otra vez

y promuevan la educación privada con los hechos que es lo que está sucediendo aquí

que eso el tribunal superior de justicia del país vasco lo ha dejado muy claro sin embargo el señor abaunza en su comparecencia en el ayuntamiento de bilbao

y ese es el problema muchas gracias eskerrik asko becerra jauna

de la misma forma que lo es decir que las obras llevan cuatro años de retraso y no me diga diez porque nosotros lo que nos corresponde como gobierno

en la actualidad se están ejecutando las siguiente obras en el distrito de ibaiondo recogidas en el plan que lleva una ejecución del ochenta por ciento

finalización prevista antes de verano ampliación de ies san adrián tres millónes financiación prevista octubre dos mil dieciocho nuevo centro

además en dos mil catorce se ejecutaron obras en el ceip iruarteta para el cumplimiento de normativa por valor de ciento noventa y cinco mil

euros a todo esto hay que añadirle un largo lista de obras menores que se han realizado como son obras en el aula de psicomotricidad y habilitación de aula de dos años en el ceip iruarteta

no tiene nada que ver con lo que usted está diciendo haur hezkuntzako eta lehen hezkuntzako ikastetxe kasuan

egun on sailburuak consejero de salud

son datos que nos han llamado la atención no es la primera vez que le preguntamos por ello

edición del ranking monitor de reputación sanitaria como bien sabe usted de setenta y cuatro hospitales que aparecen en el listado para ver los primeros hospitales vascos tenemos que ir al puesto veinticinco donde está el hospital galdakao

esta colocación en este ranking de todos los hospitales y queríamos conocer su valoración por eso le hemos formulado esta pregunta

al cual casi nadie da valor y entre lo que destaca es lo que cobran unos evaluadores desconocidos

sin visitar ningún centro anécdotas aparte la reputación de los hospitales de osakidetza de manera aislada no es

jamás lo ha sido lo que es prioritario para nosotros es la calidad y accesibilidad del conjunto del servicio vasco de salud beste modu batera esango dut

yo señor consejero con todos mis respetos no creo que se puede descalificar un ranking quizá elaborado de acuerdo a unos indicadores es la cuarto edición y no se puede

los resultados respecto a la edición anterior se han empeorado

basurto en el cincuenta y cuatro este año ha bajado al sesenta donostia sesenta y tres y el hospital donostia sesenta y seis es decir el año pasado y este año si los comparamos

hasta el puesto veintitrés el año pasado este año al veinticinco para encontrar los primeros hospitales vascos y si ponemos

del ranking en relación con lo que gastamos en sanidad que está muy bien y nosotros nos felicitamos

presupuestos de sanidad como usted bien sabe a raíz de las enmiendas que hemos presentado en estos

pues llama mucho la atención que siendo la comunidad autónoma que más gastamos en sanidad

pues no estemos en posiciones de cabeza en este ranking señor consejero llama mucho la atención que habiendo crecido el presupuesto del año pasado a este

un tres coma seis por ciento pues estas posiciones no las mejoramos cuando sistemáticamente y todos los años vemos como el presupuesto de sanidad mejora el año

euros el presupuesto más alto de todas las comunidades autónomas es algo por lo que nosotros nos felicitamos

a ello con partidas importantes que además

como usted muy bien sabe este año hemos incorporado inversiones para el hospital de eibar inversiones para centros de salud específicos para una resonancia

hospitalaria del transporte sanitario urgente en los tres territorios por lo tanto creemos que esta muy bien aportar más recursos pero creo señor consejero sinceramente que aquí usted se tenía replantear la gestión

públicos abundantes que usted dispone para gestionar en el departamento de salud

que vemos en este ranking monitor de reputación

pues no salimos muy favorecidos y es más si vemos y comparamos las posiciones que teníamos en relación con la primera edición en el que el hospital de

paradójico que año tras año vayamos empeorando cuando año tras año en euskadi se

de salud a los que ya le digo que muy gustosamente contribuye el partido popular a través de sus enmiendas eskerrik asko garrido andrea erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

garrido andrea celebro que le preocupe la calidad de la sanidad vasca yo lo comparto con usted

en el propio estudio y en su página web cita a una entidad acreditada internacional que dice al respeto al estudio y se lo voy a leer textualmente

realizados en el trabajo de revisión limitada es inferior

el citado estudio que parece que tanto le preocupa dice en su página web que paga

a los que rellenan los cuestionarios permítame mire si le preocupa que gastemos bien y estoy seguro que sí preocúpese también de que incrementen los presupuestos en las comunidades en las que ustedes gobiernan que seguro que también sus ciudadanos

nosotros hablamos siempre de calidad de satisfacción de pacientes de indicadores de resultados de estándares internacionales de objetivos

siempre estamos en las primeras posiciones pese a que algunos va el discurso por un lado pero parece que pesa la semana pasada

y euskadi junto con madrid presentaba los mejores indicadores en el mes de octubre la federación de asociaciones para la defensa de la sanidad pública

también nos posicionaba junto con navarra a la cabeza del estado euskadi lidera los programas de cáncer de cribado como reconoce constantemente la asociación española contra el cáncer el deustobarómetro que se publicó ayer y lo tiene usted hoy en la prensa sitúa

mejor valorado en euskadi estos son los reconocimientos de los que nos sentimos orgullosos y estamos seguros de que usted también eskerrik asko